erdibide honegaz ante la polémica surgida como consecuencia del procedimiento hasta ahora vigente para la inmatriculación de los bienes de la iglesia católica con la transacción que hemos firmado con los grupos euskal herria bildu y el grupo socialista perseguimos los siguientes objetivos en primer lugar queremos

y que no se hayan inmatriculado bienes de dominio público ni bienes no demaniales que no le correspondan es por ello que en vez de poner el límite en la entrada en vigor del real decreto

el límite en la entrada en vigor del real decreto mil ochocientos sesenta y siete barra noventa y ocho cuatro de septiembre

en la entrada en vigor de la constitución española de mil novecientos setenta y ocho en segundo lugar se plantea estudiar los pasos a dar en su caso para la recuperación de la titularidad que pudiera corresponder a las administraciones públicas en tercer lugar

el asesoramiento y el apoyo necesario en su caso para recuperar los bienes que pudiera corresponderles por haber sido inmatriculados indebidamente

pero entendemos que sí está abierta la cuestión de inconstitucionalidad ante posibles inmatriculaciones indebidas por parte de la iglesia católica y que tendría los mismos efectos en su caso que el recurso

realmente podría continuar con un recorrido histórico e incluso los aspectos jurídicos de todo el procedimiento y el porqué

de este modelo pero yo creo que no no procede en este momento y aunque me parece un debate realmente apasionante y que estaría dispuesto a tenerlo en cualquier momento creo que por hoy lo voy a dejar aquí porque con lo dicho creo que es más que suficiente eskerrik asko

no sé cómo calificar el debate la transacción la propuesta inicial porque a veces se alucina bastante

en fin el mundo empezó antes de franco y el registro de la propiedad en fin no sé cien años antes de franco digo porque alguno se entere algo de qué van estas cosas y

de una ley de principios de los años treinta que si quieren se leen el diario de sesiones y no es un diputado del partido popular el que lo explica lo explica otro diputado de otro partido y entonces igual así le hacen más caso

como la iglesia puso fiduciarios para que no les robaran los bienes y luego después de la guerra civil

pudieran recuperar la propiedad y lopusieran a su nombre luego cuando ustedes le hablan del decreto

es que ustedes se olvidan de una cosa el registro de la propiedad

es un registro que protege a terceros no es un registro que protege al dueño o al teórico dueño por eso lo deberían saber todos ustedes señor reyes lo ha apuntado así de soslayo verdad

pero porque usted tenga su piso a su nombre en el registro de la propiedad no implica que sea suyo da una presunción pero no implica que sea suyo y esa presunción es buena frente al tercero que compra y la legislación que había en españa

que no se podían vender porque como era un registro de bienes para vender y para proteger al tercero de buena fe que cree que le compra al titular pues había

y por eso la iglesia no tenía ni las catedrales ni muchos ayuntamientos tenían bienes propios

porque eran invendibles y por lo tanto no tenían acceso al registro porque no había que proteger a terceros

y alguien decide que eso es anticonstitucional y se modifica

para qué para que se puedan inscribir todos los bienes y desde entonces que usted sepa y que ustedes sepan las administraciones públicas

esos pueblos o ayuntamientos que usted dice están obligados a inmatricular todos sus bienes incluso los no vendibles incluso los montes vecinales están obligados es una responsabilidad suya

mancomunidades diputaciones o gobiernos están obligados hace ya más de quince años

a poner a su nombre sus bienes entonces lo que es peregrino

caso en el país vasco y no le he oído a ninguno de ustedes decirnos en el país vasco qué municipio

porque la iglesia se ha apropiado de un bien que es del municipio

en el que la iglesia ha perdido un pleito y no es contra ningún ayuntamiento es contra una empresa privada

de tercera de buena fe era tercero que había comprado a otro y dentro de ese terreno había una iglesia que luego la iglesia católica quiera inscribirla a su nombre hecho tercero de buena fe

que esté reclamando que la iglesia la haya robado nada como estamos oyendo aquí a mi señor reyes hace

en cuajo vamos a ver es la ley del partido popular

de veintitrés de junio de dos mil catorce y no ninguna enmienda del partido socialista la que dice que el artículo doscientos cuatro sustituye al doscientos seis y prohíbe a la iglesia inmatricular bienes y le voy a recordar que su partido

y le voy a recordar que cuando hace unos días se ha aprobado definitivamente esta ley que modifica el registro la ley hipotecaria

ustedes han votado en contra es que oiga no se venga apuntando aquí

que la iglesia no pudiera inmatricular más porque tiempo y lugar había tenido

en tramitar la ley pero cuántos aplazamientos de enmiendas han solicitado ustedes treinta por no contar las de otros grupos

nos viene diciendo y diciendo que se quiere poner viene usted sale aquí pone a parir la ley que ha aprobado el partido popular

oiga hasta donde yo sé y recuerde llevan ustedes gobernando en españa más de

señor que se llamaba rodríguez zapatero gobernó otros siete años

proponiendo esto en el congreso de ninguno

no venga aquí ahora encima a ponerse medallas cuando han votado en contra

incluso en la toma en consideración que ni siquiera se tomara en consideración

diciéndonos estas cosas hombre yo respeto a su enmienda

primer punto el parlamento vasco insta al gobierno vasco y al gobierno de españa a los dos qué queremos por duplicado el informe que lo pida uno al gobierno vasco otro al gobierno de españa luego los cotejamos a ver si coincide lo que hayan mandado los registradores

si ya puestos a ponernos fantásticos nos podemos ir doscientos años para atrás

no estamos hablando de regímenes políticos no tiene nada yo no sé por qué lo ponen

porque ya les digo es que como no conozco ningún ayuntamiento que se sienta ultrajado o robado por la iglesia por lo menos en el país vasco la segunda el parlamento vasco solicita al gobierno que tras la recepción del listado elabore un informe en la que se contengan aquellos bienes

de facilitar la recuperación de la titularidad que les corresponda

alucino un poco es decir en fin aquí la administración más nueva la más moderna la más novedosa es el gobierno vasco

títulos de propiedad tendría que tener sería el gobierno vasco o sea si los ayuntamientos es que además es una forma de tratar a los ayuntamientos y a las diputaciones

yo no creo que ningún sitio desde luego los que yo conozco ocurra nada semejante y la tercera pues es más de lo mismo

pues mire casi todos y la iglesia católica mire le voy a decir una cosa casi todos sus títulos han sido por donación

cuando se habla de las legítimas que la gente no sabe por qué son se pusieron cuatro quintos y solo uno

y eso le hablo hace unos seiscientos años ahora que somos más fantásticos la semana que viene vamos a traer la modificación de eso y vamos a poner que las legítimas prácticamente desaparecen van a quedar reducido a un tercio

que son tan modernos y que lo saben todo porque a lo mejor hace seiscientos años resulta que eran más listos y descubrieron que la forma de que en fin algunos no se quedaran con todo pues eran determinadas

señor damborenea ya siento que últimamente salga aquí manipulando datos las informaciones pero yo no tenía réplica cuando eso en fin

pero el principal problema de debatir últimamente con el partido popular es un problema de encontrarnos en un espacio

autismo social estamos hablando de leyes estamos hablando de algo que afecta a principios democráticos a la constitución española

a algo que va cobrando fuerza en los últimos años porque está constantemente en la prensa y usted se agarra a cosas que a eso sí que no voy a entrar porque si no no tengo tiempo pero como que tienen obligación

absolutamente falso y las administraciones públicas eso es absolutamente falso he hablado con registradores y he pedido los datos por eso para este asunto pueden no tienen la obligación

hay cantidad de edificios públicos que no han inscrito porque no bueno para empezar las calles mire por llevar en fin al estrambote el asunto

y ya está pero en fin dejando eso le decía lo de autismo social porque creo que de verdad

incapaz de percibir lo que significa que iniciativas de estas

de acuerdo grupos muy diferentes que no es no hace falta contra el partido popular es porque de verdad es algo que ahora socialmente importa mucho es algo de sensibilidad social y porque

que suponen actitudes o hechos inconstitucionales se vayan corrigiendo mire dice que tengo cuajo por hablar de las enmiendas yo solo quiero leerle el congreso de los diputados nueve de marzo de dos mil quince resumen de enmiendas y una de ellas no le voy a leer las tres que

habla precisamente disposición derogatoria derogación normativa

en aquellos extremos en que se atribuye a la iglesia católica cuando carezca del título escrito de dominio

el estado la provincia el municipio y las corporaciones de derecho público es decir lo que estábamos discutiendo cómo es posible que se admita una enmienda

no es verdad que la disposición final quinta se daba

un año para que entrara en vigor la ley solo en el aspecto referido a las inmatriculaciones de la iglesia

yo creo que fíjese que la mejor defensa hubiera sido en vez de decir las cosas que ha dicho que además

el decreto porque habla de las desamortizaciones claro nos remontamos a ciento cincuenta años atrás

que hay desafueros cometidos por la iglesia como institución con una rapacidad increíble e increíble el colegio de registradores dice que en euskadi hay cuatrocientos y la seo de zaragoza ha salido en todos los periódicos que no es ya que se acogieran por ejemplo el obispo en su momento

es que lo hizo en una forma absolutamente ilegal porque antes del noventa y ocho después de meter

de euros de dinero público a las instituciones para su reforma

no había salido el decreto del noventa y ocho atribuyéndole también la potestad de aquellos que para inmatricular aunque no fueran de su propiedad a aquellos bienes

entonces vamos a ver si nos centramos un poco en estas cosas

negar que el sol sale por el este uno puede tener sus matices y creer que el agua vaya por un cauce y tendrá sus argumentos pero cuando uno da brochazos negando evidencias es que no tiene argumentos sólidos

a usted y para acabar dice que por qué pedimos al gobierno de españa y al gobiernos vasco que reclame al colegio de notarios mire los socialistas en el congreso al gobierno de españa se le pidió que

se le pidió y dijo teniendo la dirección del registro el gobierno en el ministerio de justicia dijo él no tenía esos datos lo cual es verdad lo tienen los registradores

dijo yo no los tengo eso es autismo social eso es no querer reparar un daño eso es así

sí la verdad es que no tenía la intención de intervenir ahora señor damborenea

a pesar de las risas es absolutamente cierto no tenía intención pero ha hecho usted unas preguntas que creo que merecen ser contestadas usted decía por qué hasta la constitución pues bueno la razón es ya he intentado explicarlo antes pero no creo que lo he dejado suficientemente claro como usted sabe

mil ochocientos sesenta y siete del noventa y ocho permitía inscribir lo que ante no se podía inscribir que eran los bienes dedicados al culto pero tampoco

por lo tanto a partir de ahí sí puede haber un cierto problema de que se hayan podido inscribir algunos bienes de dominio público y no quiero remontarme hasta la desamortización porque iríamos al siglo diecinueve pero como usted bien conoce también

se vendieron para financiar las arcas y algunos se cedieron para el culto por ejemplo a las parroquias y podría caber la duda por ejemplo de si son bienes de dominio público o no por ponerles solo un ejemplo no quiero tampoco entrar ya le digo es un debate apasionante pero

por otro lado por qué hasta la constitución porque claro los que no son bienes demaniales en esos casos corre la usucapión como usted ya sabe pasados los diez años de inscripción

en ese caso la única posibilidad que quedaría sería la cuestión de inconstitucionalidad

que lógicamente tiene que ser a partir de la entrada en vigor de la constitución bueno

pero que no ha a lugar preguntaba también hablaba sobre

se pide el listado y por qué se va a enviar a otras administraciones hombre porque el listado es necesario para saber realmente

es obvio y por otro lugar también se dice que hay que ver las inversiones realizadas por la comunidad autónoma en esos bienes porque probablemente pueda dar también alguna pista sobre lo que le comentaba hace un momento de dominio público o no dominio público

al asesoramiento a las entidades locales es algo que corresponde como también usted bien sabe a las diputaciones en cualquier caso para terminar

y mejor derecho de los bienes inmatriculados por la iglesia católica consideramos

despejaría dudas sobre su mejor derecho sobre los bienes inscritos inmatriculados en cuanto a las administraciones públicas lógicamente están obligadas

para velar por la eficacia y eficiencia de las leyes así pues con la transacción que hemos firmado nosotros pensamos que ganaremos todos porque despejará las dudas que hoy existen debido a un procedimiento que ha sido cuestionado por diversos motivos pero además también por su posible inconstitucionalidad sobrevenida por lo tanto no me voy a alargar más espero haberle por lo menos contestado he tratado de contestar a lo que preguntaba

señor reyes sensibilidad social contrario a principios democráticos

sí se cumplían los principios democráticos y no había sensibilidad social claro

que han gobernado treinta y cinco años en españa que hasta antes de ayer hasta hace tres años estaban en el gobierno de españa dónde estaba su sensibilidad social y dónde estaban sus principios democráticos los ha recuperado con el partido popular bienvenido sea al club

entiendo que les moleste que les moleste que haya sido el partido popular el gobierno del partido popular el que se haya cargado ese privilegio de la iglesia siento que les moleste pero por lo menos se lo he dicho antes podían haberse abstenido

y usted me dice teníamos una enmienda que manda huevos teníamos una enmienda a la disposición adicional para que si el articulo doscientos seis seguía diciendo oiga es que el proyecto de ley si se le hubieran mirado el doscientos cuatro era el que se lo cargaba

si acaso el doscientos seis sigue diciendo esas cosas ustedes sabrán por qué han votado en contra de esa ley de la toma en consideración de la ley

aquí cuando no han hecho nada sino todo lo contrario o

esa también es para nota que tenga que salir

y en fin tiene título de propiedad lleva casi mil años

y sea muy popular en la calle a venir como vienen otros a descalificar gratuitamente a la iglesia católica que por cierto me da absolutamente igual pero podían tener

la mínima decencia cuando se refieren a otros porque a ver si aquí lo que hay que aplicar es que como el ladrón cree que todos son de su condición a lo mejor algunos pensaban que si hubieran podido hacer esto ellos lo hubieran hecho para robar